eta gizarte akordioak sustatzen el empleo es la principal preocupación de la ciudadanía vasca así lo atestiguan las encuestas como el euskobarametro de noviembre de dos mil doce

ligados al empleo y la situación económica como principal factor de preocupación

por eso el empleo es una prioridad de este gobierno vasco

es más que una mera fuente de ingresos el empleo es un elemento fundamental en los procesos de integración de socialización y de participación de una persona en la comunidad durante décadas las que abarcan buena parte del siglo pasado y lo que llevamos de este hemos construido entre todos un modelo social y económico que ha sido capaz de generar

social y económico un verdadero estado social y de derecho que ha permitido grandes niveles de desarrollo humano es un modelo compartido

por todos los países desarrollados del mundo y por los emergentes que se encuentran en vías de desarrollo no todo el mundo comparte este modelo de desarrollo y de crecimiento

y de recursos naturales no renovables se invocan y se demandan cambios de modelo cambios que se concretan poco y que no llegan a aplicarse a la escala necesaria

es el gran debate de este siglo cómo buscar modelos de desarrollo más sostenibles y que resulten satisfactorios para el conjunto de la sociedad pero en este momento y sin renunciar a avances en el logro de un modelo de desarrollo

en euskadi tenemos la realidad en la que vivimos una economía lastrada que no genera la actividad suficiente para mantener el empleo existente y para generar

y en este modelo económico en el que vivimos solo las empresas tienen capacidad real de crear empleo suficiente para atender la demanda existente en la actualidad la empresa vasca después de no pocas crisis ha seguido generando actividad empleo

es un valor importante imprescindible de esta sociedad es cierto que el sector público acoge a miles de trabajadores y trabajadoras de euskadi

de demandantes porque carece de los presupuestos necesarios para hacer tal cosa y no se trata de cinismo señora arrondo se trata de poner

y si no miren en lo que algunos hacen en municipios como orduña o en otros de su

estamos atravesando momentos muy duros y se impone ser realista en esta materia la disponibilidad de recursos de la administración está íntimamente ligada a la buena marcha de la economía existe fraude fiscal y social todo ello se persigue

no hay más recursos porque se ha reducido la actividad económica aumentar la presión fiscal para sostener el nivel de ingresos

necesitamos también hacerlo compatible con una imposición que no lastre la actividad económica la presión fiscal ha aumentado en los últimos años

pero hay que hacerlo continuo para no generar una presión mayor de la soportable por el sistema

que hacerlo sobre una economía debilitada es por lo tanto en las empresas donde debemos centrar nuestros esfuerzos y cuando digo empresas me refiero a todas sea cual sea

de las mismas sociedades anónimas limitadas cooperativas sales autónomos etcétera y cuando digo empresa también me refiero al conjunto

a quienes aportan capital y a quienes aportan trabajo porque solo entendemos la empresa como un proyecto compartido por todos y con un fin común que funcione que sea viable que tenga futuro para generar riqueza y bienestar para todos y para todas por eso nuestras propuestas de actuación

y ayudar al conjunto de personas a mejorar su empleabilidad sobre todo a quienes por circunstancias especiales tienen mayores dificultades de acceso al trabajo jóvenes

para ayudar al conjunto de las empresas este gobierno desde diversos departamentos ya está ultimando una estrategia a favor de la reactivación del empleo

es el primero de los compromisos programáticos para la presente legislatura

cuando algo tendrían ustedes que ver seguramente en el anterior gobierno que hasta el año dos mil once no puso en marcha una estrategia vasca para el empleo el plan de empleo está también en la fase final y será el propio lehendakari quien lo presente públicamente

su presentación se ha pospuesto a la celebración de este pleno porque en su contenido se tendrán en cuenta precisamente algunas de las propuestas de resolución que sean aprobadas en el mismo

necesitan saber qué hay cuál es el marco estable al que acogerse para hacer sus propios planes y sus proyectos necesitan certidumbres también sobre el marco fiscal y sobre el marco de relaciones laborales el primer ámbito no es competencia de este departamento sí lo es el segundo

que estamos en un momento de gran incertidumbre como consecuencia de la reforma laboral y de la aplicación en pocos meses de sus previsiones en materia de negociación colectiva más adelante volveré sobre este tema durante años disfrutamos

en el conjunto del estado a sabiendas de que aquella ola más tarde o más temprano acabaría rompiendo en tierra

en este momento creemos que el camino a seguir es el que definen las directrices para las políticas de empleo de los estados miembros de la unión para el año dos mil veinte la estrategia europea dos mil veinte es la respuesta a las debilidades estructurales que la crisis ha puesto de manifiesto en una economía europea

a largo plazo mundialización presión sobre los recursos

europa dos mil veinte constituye una visión de la economía social de mercado de europa para el siglo veintiuno y plantea una estrategia que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis

en una economía inteligente sostenible e integradora

de productividad y de cohesión social para ello entendemos que resulta fundamental disponer de plenas competencias sobre las políticas activas y pasivas de empleo

de la lucha contra las causas y las consecuencias del desempleo en estos momentos los datos de demandantes de empleo siguen siendo mejores que los de la media del estado

hemos resistido durante más tiempo los efectos de la crisis pero ahora el ritmo de deterioro es algo mayor según los datos de lanbide a finales de febrero

lo que supone un índice de paro del diecisiete coma cinco por ciento al inicio

con un índice del dieciséis coma seis por ciento los datos de la epa al inicio del año eran algo mejores ciento sesenta y dos mil ochocientos con un índice de paro del quince coma nueve por ciento los de la pra del eustat eran más positivos ciento treinta mil doscientos con un índice

todos ellos reflejan una realidad de grave dificultad para miles y miles de personas y de familias

la tasa de paro de menores de veinticinco años es casi del cuarenta y seis por ciento es también un dato mejor que el conjunto del estado pero es altamente preocupante es un fenómeno que preocupa a toda europa en la cumbre europea celebrada este febrero de dos mil trece

un fondo específico en los presupuestos comunitarios para atajar el desempleo juvenil estos datos negativos son el resultado de la evolución de nuestro producto interior bruto euskadi experimentó en el año dos mil ocho un descenso en su crecimiento para pasar bruscamente

que descendió un tres coma tres por ciento en el año dos mil nueve la tímida recuperación atisbada en el año dos mil diez y en el año dos mil once se ha vuelto a romper en el año dos mil doce

del uno coma siete por ciento las previsiones de evolución del producto interior bruto para dos mil trece siguen siendo negativas

en el año dos mil catorce sin embargo hay que tener en cuenta que la creación de empleo suele ir por detrás del crecimiento económico por lo que debemos esperar una no buena evolución del empleo en el dos mil trece y tampoco quizás

en esta situación urge recuperar el diálogo social para alcanzar acuerdos el estado actual de las relaciones laborales en euskadi no ayuda a generar confianza ni tampoco a generar la estabilidad necesaria para hacer apuestas de futuro

y por lo tanto la generación de empleo debemos consolidar un sistema vasco de relaciones laborales que facilite el equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresas

debe constituir el eje de las relaciones laborales en euskadi esta sociedad está necesitada de acuerdos que nos ayuden a superar la difícil situación en la que nos encontramos no vamos a renunciar a defender utilizando todas las herramientas legales a nuestro alcance la autonomía de los agentes sociales en euskadi que los mismos alcancen es más difícil que nunca pero es más necesario que nunca la reforma laboral impuesta ha cambiado radicalmente las reglas del juego

pero es una realidad que está ahí el siete de julio es una fecha cada vez más cercana qué efecto tendrá y cómo se aplicará dependerá en buena medida

para encontrar puntos de acuerdo que beneficien al conjunto de la empresa y de la sociedad vasca

de que aunque el margen de maniobra es pequeño reducido existe la posibilidad de influir e intentar llegar a puntos de acuerdo es responsabilidad de todos

no vamos a cejar en nuestro empeño por impulsar ese diálogo social para tratar de dar alguna cobertura a esas miles de personas que pueden quedar sin cobertura

sabemos que las estrategias de los sindicatos no son coincidentes en estos momentos lo que no implica que puedan ser complementarias que no haya puntos de acuerdos mínimos

es nuestra obligación y nuestra responsabilidad nosotros no queremos ni debemos renunciar a proteger los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras que este verano se pueden ver afectados por las consecuencias de una aplicación extrema de los contenidos

y nuestra estrategia es dar la cara y estar presentes en todos los foros y ámbitos donde se traten estas cuestiones la situación a nuestro juicio es grave y preocupante por eso nuestra apuesta es de país y nunca de posicionamiento partidario hay quien se escuda en otros temas que trascienden

para evitar asumir las responsabilidades que a mi juicio tienen tal y como dije en la comparecencia de febrero nosotros creemos en un modelo de empresa

en la toma de decisiones en la asunción de responsabilidades y por qué no de riesgos un modelo de empresa que facilite la formación continua la carrera profesional la mejora de las condiciones de trabajo en definitiva la mejora de la calidad de los procesos y de la competitividad los elementos clave para la mejora de la empleabilidad sobre los que podemos incidir desde nuestro ámbito de competencias son la formación y la orientación de las personas demandantes de empleo la mejora de la intermediación entre estas y las empresas y el fomento y apoyo al autoempleo y al emprendimiento lanbide

de las personas sin empleo y de las empresas no podemos incrementar la incertidumbre y la angustia

o no encuentran un primer trabajo con una tramitación lenta compleja e ineficaz no vamos a rehuir

su cometido principal debe ser ejercer la intermediación laboral entre empresas y trabajadores pasando por la adecuada orientación y formación del colectivo de personas demandantes de empleo y en constante relación con las empresas con el tejido económico de su comarca en términos generales

de determinadas tareas que dificultan esa labor de intermediación es fundamental la cercanía de lanbide al tejido empresarial y a los sectores de futuro

de formación y especialización profesional la formación deberá ir necesariamente ligada a las demandas del tejido económico ya que de esta forma se incrementará

nuestra eficacia en la lucha contra el paro en estos momentos estamos involucrados en treinta y nueve planes comarcales de empleo que prevén trescientos cuarenta acciones concretas de las que se van a beneficiar miles de personas mediante procesos de inserción laboral o formación para el empleo

recientemente firmamos el del municipio de bilbao también se ha iniciado ya el procedimiento para el plan de orientación profesional de lanbide para el año dos mil trece plan

y que prevé acciones de formación para decenas de miles de personas este mes de marzo estará publicado en el boletín

de las personas usuarias de los servicios de empleo de entre las personas destinatarias de las acciones de orientación profesional se prestará especial atención

personas jóvenes con particular atención aquellas con déficit de formación mujeres parados de largo duración mayores de cuarenta y cinco años personas con discapacidad o exclusión social e inmigrantes con respeto a la legislación de extranjería otro pilar fundamental es el conocimiento y la intensa colaboración con el tejido empresarial local por parte de nuestras oficinas esa mutua confianza entre empresas y oficinas de lanbide y ese trabajo conjunto

la cohesión social exige políticas públicas que favorezcan la integración en el mercado de trabajo de los colectivos socialmente más desfavorecidos personas con discapacidad

la inclusión activa es una estrategia fundamental para apoyar el objetivo en materia de reducción de la pobreza y desarrollo personal la ejecución de esta estrategia debe seguir desarrollándose de forma equilibrada entre los tres pilares apoyo adecuado a la renta mercados laborales integradores y

en este sentido ya anunciamos que somos partidarios de impulsar políticas de empleo inclusivo mediante la aplicación de cláusulas sociales y reservas de mercado

de acordar itinerarios de cualificación profesional que sean flexibles de elaborar planes de prospección laboral a través de la relación directa del tejido empresarial con el tercer sector

y microemprendimiento con formación y subvenciones para el proyecto empresarial y ayudas a la financiación los jóvenes están sufriendo de forma más cruda la crisis económica por una parte hay muchos que están sujetos a contratos temporales que no se renuevan por otra son muy pocas las empresas que están en condiciones de ofrecer nuevos puestos de trabajo para este colectivo

resulta difícil encontrar nichos de oportunidad para ellos el persistente aumento del paro juvenil en europa ha llevado

se decidiera dotar un fondo específico en los presupuestos comunitarios para atajar el desempleo juvenil este fondo parece que contará con una

para el periodo dos mil catorce dos mil veinte tres mil de ellos provenientes de una reasignación de fondos comunitarios

nuevos que se concentrarán preferentemente en aquellas regiones con mayores tasas de desempleo joven dos elementos a tener en cuenta en esta materia son el desarrollo del concepto de garantía juvenil sobre la oferta de oportunidades de empleo o formación a los jóvenes

dos mil trece dos mil dieciséis diseñada por el ministerio de empleo y seguridad social

tanto acciones a corto plazo consistentes en estímulos a la contratación

como acciones de tipo estructural relativas a la formación y a la educación en este contexto las medidas que prevemos para los jóvenes y

en el plan de reactivación del empleo que el lehendakari presentará en los próximos días se apuntan los siguientes objetivos y actuaciones

el apoyo de las actuaciones emprendedoras el establecimiento de programas específicos con empresas en crecimiento para incorporar jóvenes programas específicos para formar a jóvenes

promoción de contratos en prácticas vinculados a la formación mejora del conocimiento

y contemplamos también la posibilidad de facilitar la creación junto con el ámbito universitario de cooperativas júnior

para que los alumnos puedan crear cooperativas reales es decir con facturación con tributación para que se conviertan en el futuro en cooperativas de trabajo asociado necesitamos que el sistema de formación profesional sea dinámico cohesionado integrado

a nuevos objetivos nuevos métodos y nuevos sistemas organizativos por eso hemos acordado con la viceconsejería de formación profesional y aprendizaje permanente

el diseño y las directrices de toda formación profesional a lo largo de la vida laboral en estrecha colaboración con lanbide

optimizando recursos y garantizando una visión conjunta

el gobierno vasco está ultimando la definición y puesta en marcha de un programa de reactivación del empleo en el que ha tenido un papel destacado el departamento de empleo y políticas sociales programa que se presentará tan solo a menos de tres meses desde que fuimos nombrados en este nuevo gobierno de estar en un contexto de dificultades económicas pretendemos reasignar partidas presupuestarias fondos que tradicionalmente se han destinado a otros programas a este plan

en la actual coyuntura esperamos que estas aportaciones funcionen como catalizadoras de inversiones y de financiación privadas

cerrado al contrario estaría abierto a la participación y colaboración de otras instituciones particularmente las diputaciones forales para remar todos en la misma dirección la reactivación y la recuperación del empleo este plan ofrece una serie de elementos diferenciales

entre los que destacan los siguientes en primer lugar todas las acciones propuestas van a estar vinculadas muy directamente con el empleo desde tres vertientes complementarias creación de nuevos empleos mantenimiento del empleo existente y aumento de la empleabilidad

la juventud así como a otros con especiales dificultades de inserción laboral en tercer lugar se otorga un papel central al emprendimiento uno de los valores en los que la sociedad vasca debe recuperar una situación de liderazgo actualmente perdida en cuarto lugar se apuesta por ofrecer estímulos públicos que permitan incentivar y movilizar

hay un compromiso claro con la colaboración interinstitucional para producir sinergias y asegurar un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos puestos al servicio del empleo

aquellos que generarán empleo cuando se retome el crecimiento económico

reducir la dramática destrucción de empleo que se ha producido y se está produciendo en euskadi como consecuencia de la crisis económica

potenciar la integración socio laboral de las personas más desfavorecidas

como fundamento de la creación de riqueza y de empleo activar la inversión privada y las obras intensivas en la creación de empleo

a favor del empleo como se ha mencionado anteriormente el gobierno vasco presenta esta estrategia marco que recoge las aportaciones e iniciativas que el gobierno

para impulsar la recuperación del empleo es la propuesta y el compromiso que el gobierno va a poner encima de la mesa pero evidentemente una de las características estrategia es su carácter abierto flexible e integrador abierto a la colaboración de otras instituciones como decíamos especialmente las diputaciones forales y de los agentes económicos y sociales flexible flexible porque no es un plan rígido y cerrado se trata de un plan que se irá actualizando

en función de la evolución de las condiciones del mercado de trabajo y también de los presupuestos públicos y finalmente integrador porque no es exclusivo del gobierno

de inversiones públicas y privadas a favor del empleo este documento es el primer paso el plan de reactivación de empleo se va a poner en marcha por parte del gobierno

a partir de ahora se abre una fase de contraste con el resto de instituciones especialmente con las diputaciones esta colaboración interinstitucional se podría instrumentar

o bien a través de convenios específicos para desarrollar aquellas iniciativas en las que la cooperación de varias administraciones pueda contribuir a conseguir un mayor impacto

y optimización de las iniciativas de apoyo a la creación de empresas en la que las distintas administraciones pongan en común todos los recursos posibles y desarrollen de forma coordinada nuevos instrumentos para conseguir que euskadi se convierta realmente en un país emprendedor y para que las iniciativas emprendedoras que surjan en euskadi puedan desarrollarse en las mejores condiciones además de la inversión pública para reactivar el empleo en euskadi es necesario

desde el sector privado en concreto el objetivo es movilizar tres tipos de recursos en primer lugar recursos de las entidades financieras y otros instrumentos de financiación para el período dos mil trece dos mil dieciséis en segundo lugar el ahorro privado

para las empresas vascas y en tercer lugar inversión privada en rehabilitación de vivienda con criterios de ahorro energético y de sostenibilidad que sea movilizada a partir de la incentivación

en resumen y termino los ejes de actuación que este gobierno propone son financiación de pymes y autónomos fomento del emprendimiento fomento del empleo juvenil

inversión pública y como no acuerdo social eskerrik asko aburto jauna erantzunen txandan

alegrarme agradecer y yo creo que felicitarnos a todos por el tono general de este debate que ha sido

sobre todo con alguna excepción evidentemente ha sido un debate y un pleno de propuestas que podemos compartir o no

delicada situación que es nuestra obligación como parlamento y por eso haciendo un repaso muy rápido de lo que han sido las intervenciones podría decir al señor maneiro el representante de upyd que efectivamente comparto con él muchas de las apreciaciones que ha hecho en esta

sino de las políticas que se aplican y que incluso

que el propio gobierno socialista de españa aplicó algunas de ellas

que en todo caso eso que usted ha llamado la austeridad selectiva es verdad fuera los gastos innecesarios pero reforzar el gasto y la inversión necesaria

propuesta socialista para pedir su derogación y de las otras cosas que ha ido desgranando pues vamos a ir viendo en la negociación de las resoluciones el grado de acercamiento que puede haber entre ellas lo mismo diría a la representante

bildu con la que yo creo que hay un buen fondo de coincidencia partiendo del

que ella describía y que nosotros compartimos que es la de crear empleo de calidad en este país y luego hacía una serie de consideraciones que pueden ayudarnos a ello la administración como creadora de ese empleo de calidad yo lo he dicho esta mañana

que tenemos que formar parte activa de esa creación de empleo y no solo

ha hablado de fiscalidad de financiación de créditos del papel de las entidades financieras

economía social cuestiones en las que podemos coincidir y lo vamos a ver esta tarde luego hay otras cosas

ya lo saben todos no coincidimos que forman parte de esos mantras que repiten habitualmente están en contra de las

y a favor de las inversiones en infraestructuras sociales es que no son incompatibles

inversión en infraestructuras sociales en educación en sanidad pero hacen falta también infraestructuras logísticas que sirvan

de nuestras empresas de las personas de nuestros productos

con otras de carácter social y otro de sus mantras habituales que es el marco propio de relaciones laborales mire la prioridad hoy es cambiar

y menos exclusivos y excluyentes y si quiere cambiar esas regulaciones nosotros estamos dispuestos no a otra cosa

la representante de los nacionalistas vascos puedo decir

buena parte de las cosas que ha dicho y que a propuesto hablaba de autónomos y pymes de la financiación que hace falta

de la contratación de personas en paro con ese fondo social por el empleo de un plan de empleo para jóvenes de los contratos de formación en prácticas del aprendizaje durante toda la vida

de los planes de rehabilitación de viviendas es que la mayoría de esto ya existe estoy tan de acuerdo que se podría poner continuar con por ejemplo este último el de rehabilitación lo pusimos en marcha en los tres primeros meses de vida del anterior gobierno con el plan más euskadi

le falta alguna cosa ustedes son el partido del gobierno por lo tanto le hace falta hacerlo

pero el gobierno tiene ya que venir aquí con concreciones con propuestas concretas que recojan los recursos que vamos a destinar que este gobierno va a destinar a cada una de estas actuaciones a cada uno de los proyectos y de las medidas a qué personas va a afectar

ya un gobierno y un partido de gobierno les falta la concreción en todos estos asuntos porque en las definiciones seguro que

poner de acuerdo en buena parte de ellas lo mismo que con el representante del gobierno con el que sí que tengo dos asuntos que han

del inicio de su intervención que no comparto en absoluto

solo las empresas tienen capacidad para generar empleo ya las empresas solas no tienen capacidad para generar empleo

desde lo público que les facilita un entorno que les facilita en ocasiones financiación que les facilita infraestructuras

pero es que además se contradice con alguna de las propuestas que el propio grupo nacionalista ha dicho aquí la administración como generadora de empleo

solventar y paliar situaciones de colectivos que están en especial dificultad en este momento y la segunda cosa que no comparto y a veces se convierte en la gran mentira

es que este problema que tenemos es un problema de gasto y no de ingresos luego explicaré lo que ha dicho usted para relacionarlo con esto

si no cómo es posible que lo que hemos construido en este país el estado del bienestar la educación pública la sanidad pública el sistema de pensiones de protección social lo pudimos construir y sostener cuando la renta per capita en este país era de

muy mal repartido los recursos y la riqueza y está muy mal repartido entre otras porque la fiscalidad está muy mal

muy injusta y no reparte también las cargas en función de los recursos de cada uno porque lo decía antes la fiscalidad ha ido tendiendo

sobre las rentas de trabajo fundamentalmente y sobre los impuestos indirectos y eso es radicalmente injusto y además si les sumamos

más la bajada de tres cuatro puntos de esa presión fiscal en los últimos años en los años

no es problema de ingresos es que hemos ido abandonando la razón de ser o una de las razones de ser también de la política fiscal en este país

y tener recursos suficientes para hacer lo que tenemos que hacer para construir el país que queremos por eso no puedo compartir de ninguna manera esa apreciación suya de que el problema no es que tengamos menos por la política fiscal sino por la caída de la actividad económica también por eso pero sobre todo por una política fiscal equivocada durante mucho tiempo y caso aparte ha sido la intervención de la señora quiroga la representante del partido popular

que se ha olvidado de leer el libro usted ha venido aquí a defenderse no ha proponer absolutamente nada y la verdad es que lo lamento porque yo no pretendía hacer de este debate de ninguna manera

pero lo que ha ocurrido es que cuando yo he descrito las cuestiones las cosas los problemas que nos están llevando a una situación de ruina

por algo será porque ustedes son precisamente los defensores de esas políticas que nos están conduciendo

y a la pobreza a miles y a millónes de personas qué es lo que no puede entender de este pleno monográfico que este parlamento

al principal problema que tiene la ciudadanía vasca que este parlamento y los grupos parlamentarios cumplamos con nuestra obligación de dar respuestas a lo que está sucediendo

mire revíselo si se fija en lo que yo he dicho esta mañana y en las propuestas que el grupo socialista va a presentar a la tarde

son la consecuencia de ese plan son reforzar precisamente

en ese plan muchas de las cuales por cierto ha expresado también el nuevo gobierno como si fueran cosas novedosas cuando ya están recogidas en él y luego se ha dedicado como se daba por aludida se ha dedicado a defender en primer lugar

casi apasionada la reforma laboral claro pero es que el problema es que usted mismo ha dado los datos de lo que ha significado esa reforma laboral resulta que desde que está en vigor

en euskadi pero bueno es que qué esperábamos de una reforma laboral que lejos

lo que hace es abaratar el despido qué esperábamos de una reforma laboral que despoja de todos los derechos a los trabajadores y otorga a los empresarios la potestad

y su futuro qué es eso que nos dice esta reforma que cualquier empresario cualquier empresa que reduzca beneficios beneficios no pérdidas puede despedir trabajadores el abandono de los convenios colectivos para dejar a la intemperie a los trabajadores

aprobar sin ningún acuerdo sindical sin ningún acuerdo pero qué esperábamos de una reforma laboral

en euskadi por eso repito nuestro objetivo con esa reforma simplemente derogarla y es lo que vamos a pedir a este parlamento que impulse esa derogación usted puede estar muy orgullosa de que mejoremos competitividad bajando salarios y recortando derechos bueno pues a mí me parece un drama un drama

cuando comprobamos que todo aquello que nos puede permitir ser de verdad más competitivos de manera digna la innovación la investigación las inversiones en proyectos

las de valor añadido han desaparecido de las políticas del gobierno del partido popular es decir está claro el partido popular apuesta por precariedad por menos derechos por desmantelamiento por recortes de servicios públicos de políticas sociales de eso que de verdad procura igualdad y bienestar en la sociedad y ustedes lo que apuestan es por lo que decía antes recorte recorte y recorte ese es su modelo

voy acabando además nos dice no ha hablado de brotes verdes pero casi

el dos mil trece ya es el último año malo y el dos mil catorce revíselo porque es que resulta que sus amigos europeos han venido aquí a decir que igual hay que rebajar las condiciones que tiene que cumplir españa porque el dos mil catorce va a ser peor

me puede decir de dónde saca que vamos a crear empleo en qué sectores cómo

dónde están las empresas de corte tecnológico que lo van a hacer dónde están los proyectos tractores en españa para poder hacerlo dónde las inversiones

usted se ha dedicado a defenderse de todo esto a criticar al partido socialista y por cierto ni una propuesta ni una sola propuesta ha pedido al gobierno que haga un plan pero me puede decir es que igual no lo he oído pero he estado muy atento me puede decir una sola propuesta que usted haya presentado hoy aquí en esta tribuna puede estar muy orgullosa de la reforma laboral que destruye empleo

puede estar muy orgullosa de la reforma educativa que tiene menos becas menos investigadores menos profesores ya pero de qué está hablando aquí hoy dónde están sus propuestas de verdad

tenemos una oportunidad de oro para que este parlamento dé respuesta a lo que está pasando en este país no debemos desaprovecharlo eskerrik asko lópez jauna

sí muchas gracias presidenta en primer lugar tengo que decir que es un gusto participar

realmente interesan a los ciudadanos y seguramente aquellos ciudadanos que estén siguiendo este debate que quizás no sean muchos pero los que a partir de hoy a la tarde

de cosas importantes pues seguramente se sentirán más orgullosos de lo que se sienten ahora de su representantes políticos y por eso digo que creo que es un gusto poder hablar del problema fundamental que tiene

en numerosas ocasiones en este parlamento se tratan asuntos de un interés bastante menor por lo tanto

hablar y discutir y también incluso criticar determinadas medidas que se han aplicado desde este gobierno

creo que es importante y que nos vean acordar también creo que eso es importante acordar

aprobar medidas para salir de esta situación desde luego la

el debate político y la política es absolutamente fundamental para salir de esta situación en la que nos encontramos en fin todos hemos aportado datos compartimos que la situación es

muy complicada pero también es interesante lanzar un mensaje de optimismo

también se pueden articular medidas para salir de esta situación y deberíamos dejar de no dejar a un lado las críticas que son absolutamente legítimas pero sí dejar a un lado intereses partidarios para

mayor apoyo posible poder como digo impulsar

imprescindibles por lo tanto todos compartimos que la crisis económica y el desempleo son el principal problema de euskadi ahí están los datos

y estamos sufriendo una crisis global terrible que nos afecta hay quienes señalamos que la crisis económica en españa tiene particularidades y que también euskadi tiene particularidades y sin duda que a la crisis económica en el conjunto de españa se suma una crisis política social e institucional

para resolver la crisis económica que venimos sufriendo hay que resolver también la crisis la crisis política la crisis institucional la crisis incluso de la política y de los partidos políticos y de los representantes políticos hay que resolver todo eso

y vamos a salir de la crisis todos juntos al menos eso es lo que nosotros queremos hay quienes también ponemos sobre la mesa

y traemos a este debate críticas yo creo que más que razonadas a las políticas y decisiones económicas absolutamente desastrosas y profundamente injustas aprobadas por el gobierno central en los últimos meses y a las que

debería añadirse nosotros no tenemos ningún problema habría que añadirse

la política económica del señor zapatero fue un absoluto

es legítimo hacer esas críticas y que hacer esas críticas es útil porque estamos a tiempo de cambiar esas políticas profundamente injustas tomadas por parte del gobierno central en los últimos meses también criticamos

las últimas reformas laborales impulsadas por los últimos gobiernos centrales especialmente la última reforma laboral que solo ha servido para facilitar y abaratar el despido y para laminar laborales y derechos sociales esto es una realidad y por lo tanto hay que recordarlo y podemos criticar también al gobierno vasco anterior por no haber impulsado las medidas necesarias suficientes y necesarias para salir de la crisis de lo que también es responsable

obviamente del país vasco que apoyó al señor lópez y sus políticas hasta que le vino bien dejar de hacerlo y también esto es cierto también esto es verdad también ustedes son corresponsables de no haber hecho

este gobierno podía haberlo hecho para salir de la crisis y podemos criticar la inacción del gobierno actual su parsimonia en la toma de decisiones

y aprobar cuanto antes las mejores iniciativas posibles y creo que hoy se van a aprobar buenas iniciativas y en las próximas semanas también el gobierno vasco

lógicamente estudiaremos a fondo para que pueda servir para dar utilidad a los ciudadanos y salir cuanto antes de esta situación desde luego el máximo responsable para liderar la salida de la crisis es el gobierno actual

no es upyd la responsabilidad mayor

el gobierno vasco y por lo tanto nosotros le exigimos que ejerza esa responsabilidad y que nos traiga cuanto antes ese plan ese programa esas medidas concretas

propuestas de resolución basadas en mi discurso inicial aprobaremos apoyaremos estas propuestas de resolución y todas aquellas

oposición a la reforma laboral impulsada por el gobierno central

propuestas para el mantenimiento del estado del bienestar y de las políticas sociales

a la internacionalización de nuestras empresas al emprendimiento a la formación a la innovación al autoempleo a los proyectos tecnológicos planes de choque para crear empleo

el apoyo a inversión pública para crear empleo y el impulso público para incentivar la actividad económica

pondremos encima de la mesa la necesidad de plantear una reforma integral de la fiscalidad para hacerla más justa y progresiva y para que sirva para obtener más recursos pensamos que este es un asunto importante que hoy también puede ser a debate y desde luego la implementación cuanto antes y aprobación de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y medidas relacionadas también con el mercado de trabajo

algunas de estas medidas entre ellas el contrato único indefinido con indemnización creciente que nosotros hemos venido defendiendo en los últimos meses para su aplicación en el conjunto de españa y otras más genéricas referidas al estado autonómico o al entramado institucional vasco pues

que son un freno evidente a día de hoy para salir

irán nuestras propuestas de resolución parece ser que el grupo nacionalistas vascos va a presentar veintisiete la señora quiroga va a presentar más de cien al parecer eso le he entendido el grupo socialista más de cincuenta nosotros

estudiarlas y apoyaremos todas aquellas medidas planes propuestas concretas que vayan en la línea de nuestro discurso y todas aquellas que sirvan para impulsar la actividad económica y la

vasco traiga aquí su plan nos explique su plan nos explique su programa

para salir cuanto antes de esta situación nada más y muchas gracias

gracias señora presidenta

en esta réplica tanto el señor lópez como el señor maneiro

han dicho que me he dado por aludida parecería que por el embarazo

han denostado una y otra vez la reforma laboral y han aludido a la reforma laboral y usted entenderá que el partido popular

una reforma complicada dura que nos hubiera gustado

tener más apoyos pero que la responsabilidad de los demás

y se ha optado por la demagogia cuando realmente y yo vuelvo a repetirlo se nos está responsabilizando al partido popular y al gobierno de mariano rajoy de este último tramo del aumento

cuando yo quiero recordar de dónde venimos y cuales han sido las políticas que se han aplicado y realmente señor lópez es que nosotros estamos encantados de debatir sobre empleo y creo que este parlamento

por supuesto pero es que usted ha utilizado esta mañana la tribuna para desarrollar un concepto

con recetas viejas porque le vuelvo a recordar que es que ustedes han gobernado durante todos estos años que todas esas cosas malas que usted dice

y que nosotros ahora tenemos que dar la vuelta para poder crear empleo

saben que esto es así y pueden repetirlo una y otra vez pero es que usted señor lópez no tiene credibilidad igual que no tiene credibilidad cuando ahora nos plantea una serie de iniciativas que está en todo su derecho y por supuesto lo puede hacer cuando hasta hace tres meses estaba gobernando

en mi primera intervención insisto es un debate necesario es un debate que en este parlamento se tiene que producir y seguramente se va a producir más veces pero que nos hubiera gustado que fuera el gobierno

y esto es lo que también he dicho en mi primera intervención que es responsabilidad de este gobierno

un plan de empleo qué es lo que piensa hacer en los próximos cuatro años para crear empleo pero después de escucharle al señor consejero

que se lo trasladen nos ha dicho que hasta el dos mil catorce no se va a crear ni un solo puesto por tanto nos preocupa

el principal problema que hay en euskadi que es la creación de empleo eso sí nos ha dicho que van a hacer un plan para poder acceder a no se sabe qué fondos europeos que eso sí que los necesita y los quiere para euskadi por tanto

es que no estamos en el momento de los discursos que esos ya han pasado

lo que le pasa a usted es que no le han pasado nuestras propuestas

son noventa propuestas lo que pasa que tampoco hemos tenido las suyas porque no le interesa nuestro voto ha ido

a llevárselas porque estamos en otro juego estamos en otra situación y eso es lo que los ciudadanos ven

que en esta situación en la que estamos con ese número de desempleados aquí se esté jugando a otras cosas y no se esté a buscar soluciones a los problemas

a otra intervención porque aquí los papeles como he dicho aguantan todo

y los cuerpos aguantan todas las camisetas pero lo que nos piden también es responsabilidad y ya no estamos en tiempos con las camisetas y en las manifestaciones porque ya hay algunos que tienen responsabilidades de gobierno ya están gobernando en gipuzkoa ya están gobernando en san sebastián y mire

si ustedes se están oponiendo a todas las reformas del gobierno de mariano rajoy

el número de desempleados son cincuenta mil cuatrocientos setenta y dos personas rebasando el listón de los cincuenta mil por primera vez desde marzo de mil novecientos noventa

a febrero de este año han subido en setecientos cuarenta y nueve las personas desempleadas le hace mucha gracia pero no tiene ninguna gracia porque como le digo

por lo tanto algo está fallando y la alternativa de bildu no crea tampoco empleo

más o menos de acuerdo pero son momentos en los que ya no caben esos discursos

lo que hay que hacer es plantear cosas concretas y eso es lo que le estamos pidiendo precisamente al gobierno vasco

y lo que estamos pidiendo y es que si como ha dicho el señor consejero ya existe un documento que

por qué no se trae al parlamento dónde está ese documento si está tan claro cuanto antes hay que ponerlo en marcha porque sino no es creíble toda la campaña electoral y todo lo que nos han dicho desde el gobierno vasco que estamos en una situación de emergencia que ustedes lo tenían todo clarísimo y que desde el minuto uno sabían lo que iban a hacer y luego también me da pena que no esté el señor consejero porque es

también ya hay discursos que pues ya uno no lo puede mantener igual que antes es verdad que cuando está gobernando la responsabilidad

y su preocupación de las consecuencias que podía tener a partir

claro cuando este consejero ha hablado de una imposición de la reforma laboral y este gobierno acaba de

que no lleva consenso por tanto se podría considerar que es una imposición y además las consecuencias que pueda tener

pues ya hay discursos que no se mantienen pero bueno bienvenidos a la responsabilidad bienvenidos a lo que es gobernar tomar decisiones y así probablemente empezarán a entender la dureza de esta situación pero

aquellos representantes aquellos políticos que asumen su responsabilidad

y que son capaces de tomar decisiones duras decisiones complicadas y no de aquellos que se mueven en la demagogia porque los discursos

por tanto yo termino mi intervención señorías recordando las propuestas que ha planteado el partido popular que están a disposición de todos los grupos parlamentarios para que las puedan ver le tengo que decir señor lópez que no hemos dejado prácticamente nada de espacio a esos grandes principios y grandes ideas

sino que son medidas muy concretas medidas que se pueden aplicar desde ya a la economía y termino diciendo lo que he dicho también en mi primera intervención que el partido popular está dispuesto

tenemos que tener algo sobre lo que posicionarnos y este gobierno todavía no nos ha planteado nada sobre lo que posicionarnos

no tenemos unos presupuestos por tanto no es una cuestión de que queramos decir que este gobierno está despistado es que los hechos

que no están haciendo nada porque no contamos todavía con ningún documento y fundamentalmente y termino con esto con los presupuestos porque todas estas medidas todos estos planos a los que se ha referido el señor consejero

no tenemos vergüenzas que tapar las camisetas no son para tapar vergüenzas son para sacar y manifestar aquello que la mayoría de la sociedad está viviendo está viendo es la gente

eso estamos defendiendo y unos servicios públicos de calidad que ustedes

ha sido una asunción de todo lo que hace madrid y nada más

egindako politikaren ondorioz ere y hablando de gipuzkoa los datos se pueden utilizar de cualquier manera pero sin demasiada demagogia la tasa de paro en este momento

los puestos de trabajo públicos y se están no solamente manteniendo y ampliando y se están haciendo unas políticas sociales que deberían de ser el ejemplo del gobierno vasco también partido socialista

parece de verdad que no ha gobernado nunca egin behar da hay que hacer baina zer egin da orain arte

es un mercado que hay que defender para euskal herria bildu

desregulado y no queremos un mercado desregulado para nada

otras propuestas que ha planteado que podemos compartir seguramente y que nos hubiese gustado que las hubiese puesto en marcha mientras ha estado también en el gobierno en vez de recortar

esenciales eajri

ez da guk diogu que el sector público puede hacer mucho más que lo que está haciendo y puede para empezar no destruir

acaba de decir el tribunal veintinueve designaciones ha dado en el ayuntamiento de bilbao

lo que se ha hecho es poner límite a esos despropósitos a las asignaciones a dedo no equivoquemos las cosas

presión fiscal estamos siete puntos por debajo de europa todavía de la media europea y en los últimos años no se ha ido a mejorar

al contrario solo en los últimos meses se han empezado a dar algunos pasos es necesaria una reforma fiscal también mirando

orden socio económico impuesto es el resultado

humanas en instituciones humanas las decisiones pueden modificarse las instituciones pueden modificarse y en caso necesario

señor lópez han encontrado el filón de los monográficos entendemos que con ello pretenden convertirse en este caso en los defensores del empleo

pero como bien ha dicho usted hace falta el impulso y acuerdo de todos coincidimos

vasca de empleo dos mil once dos mil catorce se presentó como un buen plan para generar empleo

económica y progreso dicha estrategia fue presentada a finales de diciembre de dos mil once dos años y medio más tarde de haber llegado al gobierno

otros grupos no hayan hecho ninguna mención a la misma ni hayan solicitado su desarrollo de que después me ha achacado a mí que en todas las medidas y todas las propuestas que hemos hecho sería suficiente con desarrollar lo que ya pusieron en marcha desde su gobierno pues entonces haberlo solicitado no era necesario este pleno monográfico ni nada por el estilo una pnl para que se desarrollará lo que ustedes ya habían hecho

se comprometió a presentar un plan de choque contra el empleo porque entendía que era lo prioritario dicho plan como ya se ha dicho también por parte del consejero está preparado

pero en un acto que le honra el actual gobierno ha decidido esperar a presentarlo para poder incorporar al mismo las propuestas de resolución que se aprueben hoy en este parlamento por mucho que ustedes lo repiten tanto ustedes como partido popular

que este gobierno está parado tiene preparado

tiene preparado un borrador de proyecto de presupuestos que por cierto esos presupuestos que ustedes no quisieron presentar por lo que adelantaron la convocatoria electoral repito cien días después todavía ni han pasado después

cuando el procedimiento habitual para los presupuestos y usted lo sabe bien lleva entre cuatro y cinco meses por lo tanto que no le quede la menor duda señor lópez y a la señora quiroga también le digo lo mismo que este gobierno avanza y trabaja y además tiende la mano a todos los grupos para trabajar conjuntamente pero si lo que verdaderamente pretenden es criticar la reforma

laboral de mariano rajoy en la que ha centrado gran parte

en el segundo turno se han equivocado de foro esto no es el congreso de los diputados

el grupo vasco fue contundente en sus criticas a la reforma aprobada por madrid esperemos el

ahí nos encontrarán respecto a la fiscalidad ya discutimos largo y tendido en el anterior pleno monográfico por lo tanto no voy a entrar a debatir sobre este tema sobre el que varios de los grupos también

quiero hacer dos apuntes esta perentoria necesidad de modificar la política fiscal que ahora se ha convertido

recordarle como ya se hizo en el monográfico anterior ha sido aprobada siempre

con el voto del partido socialista por lo tanto no entendemos ahora si dónde dije digo digo diego y respecto al tema del

digan dónde quién denuncien los casos concretos pero no vale

diciendo que existe que existe y creando esta alarma social se ha dicho por activa y por pasiva y todos los grupos creo que compartimos

pero sin crear ninguna alarma social una respuesta concreta a una de las cuestiones que ha planteado aquí a las diferencias de ingresos de la población vasca tal y como se recoge en la encuesta de pobreza y desigualdades sociales por cierto elaborada por su gobierno el índice

puntos por debajo de la unión europea y casi diez puntos por debajo de españa euskadi y españa son dos realidades distintas también

trabajemos por esta senda para seguir disminuyendo dicha diferencia pero tampoco seamos alarmistas y catastrofistas porque la situación evidentemente

pero hay que utilizar los datos ciertos y comparables por último respecto a las criticas sobre control de déficit austeridad

creo que antes de intentar convencernos a todos nosotros de sus nefastas consecuencias debiera hacerlo con su compañero de partido el comisario europeo señor almunia defensor a ultranza de todas estas medidas respecto al representante de upyd que aunque no se encuentra en la cámara

compartimos con él que es al gobierno vasco a quien le corresponde liderar y presentar el plan y las medidas necesarias para generar empleo y actividad económica en definitiva

me remito a lo que le he dicho al representante del partido socialista el gobierno trabaja

ante la insistencia de celebración de este pleno y a pesar de que compartimos con el señor maneiro que a quien le corresponde liderar el plan de empleo es al gobierno ha preferido esperar para poder incorporar las propuestas de resolución que hoy se aprueben aquí en cuanto a la señora quiroga representante del partido popular su intervención se ha basado en defender la reforma laboral de rajoy por lo que repito lo que le he dicho al señor lópez no con dicha reforma laboral como ya expusimos en el congreso de los diputados y solo esperamos que el pronunciamiento del tribunal constitucional deje sin efecto aquellos aspectos más contestados y mientras trabajaremos como ya ha dicho también por velar para que hagan el menor daño posible al mercado laboral en su conjunto compartimos con ustedes la respuesta que le han dado al señor lópez cuando hecha la culpa de todos los males de euskadi y del estado al supuesto modelo neoliberal olvidándose

han estado en el gobierno en euskadi y por cierto el empleo se ha destruido de forma brutal lo cual evidentemente no les achacamos a ustedes pero que hay que tenerlo en cuenta también y

en el estado ya hemos contestado y se lo

el plan de choque para el empleo pero por respeto a este parlamento

esperar para poder incorporar las propuestas de resolución que hoy se aprueben también compartimos y como ya hemos dicho en la primera intervención

sabemos lo que es gobernar tomar decisiones y no se preocupe señora quiroga que tomaremos todas las decisiones que sean necesarias para sacar este país adelante

no compartimos que no sea necesario un plan de choque para el empleo ni de reactivación económica como defendía el señor garitano en gipuzkoa esa afirmación

cuando tampoco eran necesarios planes de industrialización para regenerar la industria que el tiempo se ha encargado de demostrar que fueron imprescindibles e incluso

compartimos con ustedes en que es necesario avanzar en conseguir un modelo de relaciones laborales propio eta horretan lan egiteko prest gaude arrondo andrea

konpromezuarekin no se ha firmado ningún convenio este